muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señores consejeros buenos días señor lehendakari el pasado día

interpelación al consejero de salud al objeto de que nos pudiera explicar la posición del gobierno y de su departamento en relación al proyecto de construcción

y en general su posición en relación al instituto de investigación biosanitaria llamado a ser el mayor de euskadi y uno de los más punteros de españa hoy defendemos la correspondiente moción y la transaccional

junto con el grupo popular y junto al grupo socialista que recoge creo que

por los diferentes grupos que han mantenido una posición coherente en este aspecto en las últimas semanas y que vienen a defender

sin duda alguna una exigencia al gobierno vasco para que no paralice un proyecto que nosotros consideramos absolutamente fundamental para la investigación biosanitaria o al menos no lo haga con el nihil obstat de la oposición parlamentaria o al menos

esta transaccional decíamos en aquella interpelación que el departamento de salud parece querer abandonar la construcción del edificio que serviría de sede a biocruces

el mayor del país vasco y uno de los más punteros de españa algo que

del gobierno y la propia enmienda del grupo nacionalistas vascos presentada

ha confirmado no entramos o no queremos entrar al menos por nuestra parte a valorar

otros gobiernos lo importante es qué decidimos hacer a partir de ahora es decir cuál es nuestra apuesta qué hacemos a partir de ahora en nuestra opinión lo que debe hacerse está perfectamente recogido en lo que hemos firmado

en esa enmienda transaccional que ustedes tienen o tendrán en breve en sus manos decíamos en la interpelación que el gobierno vasco

cuando el proyecto se hallaba en una fase muy avanzada de licitación

muy favorables que ahora habría que devolver con la correspondiente indemnización y ayudas comunitarias a fondo perdido que jamás se llegarían a ingresar en fin

mucho la comunidad investigadora está ciertamente preocupada y cree que tal decisión supondría un freno a su labor y echar por tierra

dejarla malherida el departamento de salud

que estaría o debería estar dotado de tecnología puntera y dos animalarios

para los setenta grupos de trabajo adscritos a biocruces para liberar este espacio las autoridades sanitarias cuentan con el traslado de los laboratorios al nuevo

que se inauguraría próximamente esta solución desde luego no satisface a los investigadores y tampoco a nuestro grupo

para sus propósitos y necesidades y porque estarían al fin y al cabo uno de los objetivos del proyecto biocruces era integrar a todos los grupos de investigación que funcionan vinculados al hospital desde hace treinta y cinco años

tal decisión y esto ciertamente nos preocupa mucho podría suponer no lograr la certificación como centro de excelencia para biocruces

mayores vías de financiación para mantener la actividad investigadora esta decisión del gobierno vasco ciertamente nos parece sorprendente por mucho que

del nuevo edificio a nosotros nos parece absolutamente prioritario

debería quedarse al margen de excusas

proyectos como este nos ayudarán o nos ayudarían a salir de la crisis y es en esto en lo que tampoco se debe recortar ni poner dudas

de pretender paralizar el proyecto va a suponer tener que devolver el prestamo de diez coma cinco millónes de euros solicitado por el anterior consejero de salud el señor bengoa

además la renuncia a la sede de biocruces supondría también tener que renunciar a las ayudas de los fondos feder europeos

esta decisión que nosotros pretendíamos evitar con esta moción podría suponer

biomédica un freno a la llegada de científicos

aquí se nos marchen y esto es ciertamente grave la fortaleza del proyecto estaba avalada por el gobierno de españa a través del instituto carlos tercero

y por las instituciones europeas sin embargo el actual departamento ha dejado en el aire incomprensiblemente este proyecto decía en su respuesta a la interpelación el consejero que este gobierno no va a dar un mazazo a la investigación ni a la sanitaria ni a ninguna otra sin embargo

a los hechos nos remitimos y al proyecto de presupuesto que este gobierno ha presentado también plagado

también en materias relacionadas con la investigación y en materias relacionadas con aquellas partidas que deberían facilitarnos la salida de la crisis

un futuro mejor para todos hablaba el consejero del momento de oportunidad y de la crisis económica y también hablaba y recordaba el compromiso histórico de euskadi

nosotros pensamos que no podemos vivir del pasado debemos continuar por ese camino y mejorarlo y este gobierno

en esa senda y votar a favor de esta moción que hemos presentado en lugar de seguir la senda claramente equivocada de otros gobiernos incluido el gobierno de españa de laminar todo lo relacionado con la investigación y el desarrollo es decir con todo aquello que debería mejorar nuestro presente y también poner las bases de nuestro futuro hablaba también el consejero optimizar costes unificar estructuras para a continuación insistir en aquella interpelación en la situación de crisis económica en la que nos encontramos y las estrecheces presupuestarias para justificar lo que el gobierno llama la necesidad de reenfocar el proyecto al fin

recortes en asuntos que no deberían ser recortados al parecer en este debate en este punto en esta ocasión va a contar con el apoyo del grupo

en algo que nosotros consideramos fundamental para poder salir de la crisis de la mejor manera posible y poner las bases de nuestro futuro

que creemos recoge lo fundamental de lo que debería hacerse hemos firmado esta transaccional con el grupo popular y con el grupo socialista a los que agradezco

moción inicialmente planteada quede claramente mejorada por esa transaccional que hemos firmado los diferentes grupos y que consta de unos cuantos puntos en primer lugar lo que se propone es que este parlamento inste al gobierno vasco

y el desarrollo en todos los ámbitos proponemos instar al gobierno vasco a mantener proyectos de investigación en marcha que ya cuentan con garantías de financiación como el instituto biocruces proponemos que este parlamento inste al departamento de salud a que revoque cualquier tipo de orden e indicación que haya dado para paralizar los proyectos puestos en marcha

para restaurar por un lado el carácter estratégico de la colaboración entre la upv y el instituto biocruces la incorporación de los investigadores biomédicos

la actividad de la unidad de biomedicina cuantitativa el desarrollo de la sala de terapias avanzadas con células madre el proyecto del animalario el proyecto de construcción con el edificio central el equipo de dirección científica que ha diseñado el proyecto científico de biocruces

las acciones necesarias para alcanzar la acreditación necesaria para su constitución como instituto de investigación con personalidad jurídica propia y proponemos que este parlamento inste al gobierno a compartir y acordar con todos los agentes implicados este

en colaboración con el resto de centros de investigación de la comunidad en fin creo que es una transaccional que mejora la propuesta original muy completa y muy necesaria y sería interesante que una mayoría de parlamentarios votaran a favor de ella cosa que al parecer no va a ocurrir

al gobierno vasco para impulsar estos recortes de los que estamos hablando relacionados con el instituto biocruces tengo aquí

la carta de dimisión de la dirección científica de biocruces que se envió al señor consejero

ponía en valor el instituto de investigación biomédico

constituido formalmente el diecisiete de febrero de dos mil doce seguro que ustedes también tienen esta carta

todo lo que se ha hecho hasta ahora y todo lo que se podría hacer si se mantuviera en pie

del departamento de salud ha rehusado reunirse formalmente con la dirección del instituto al objeto de informarse adecuadamente de la marcha del mismo por el contrario el actual consejero del departamento de salud

de forma taxativa su indicación de que pongamos fin de forma inmediata

y que reclamamos en esa enmienda de transacción entre ellos el proyecto de construcción del edificio central del instituto biocruces es por lo tanto la carta de dimisión del equipo

donde efectivamente termina diciendo que consideramos que biocruces carece de un apoyo del departamento de salud se pretende vaciar de contenido su proyecto científico y se cuestiona su acreditación por lo tanto y en conclusión terminan diciendo que la dirección científica de biocruces al completo obligada a presentar su dimisión en fin más claro creo que no puede estar

también los miembros del comité científico externo de biocruces han mostrado su apoyo a este proyecto y han sido ciertamente

de salud dicen que como miembros del comité científico externo del instituto biocruces queremos manifestar nuestra preocupación por la situación en la que se encuentra el instituto

que se puede perder una gran oportunidad para poner en pie un instituto de investigación sanitaria de referencia en la investigación biomédica y reconocido por el instituto de salud carlos tercero solicitamos que las autoridades competentes en estas decisiones

tiene impulsar las investigaciones biomédicas en defensa de la salud de las personas y su repercusión en el desarrollo económico y tecnológico del país

son como digo palabras del comité científico externo

nos estamos jugando mucho y en estos momentos de crisis económica

no hay que dar ni un paso atrás en los avances que se han producido en los últimos años no se pueden impulsar recortes en estas materias tan sensibles por lo tanto y para eso solicito el apoyo de los grupos de la cámara

esta mociónque nosotros consideramos absolutamente fundamental tenemos que obligar al gobierno vasco entre todos a que no dé marcha atrás y que defienda

el presente y el futuro del instituto biocruces nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

firmemente a seguir apostando apoyando promoviendo y fortaleciendo la innovación y la investigación en materia sanitaria

dentro de la política general de la promoción de las actividades

bigarrena a que se comprometa a dotar al instituto de investigación sanitaria de biocruces

humanos y financieros suficientes para desarrollar su actividad investigadora promoviendo además la participación y la colaboración con el resto de agentes del entorno que trabajan en el ámbito de la investigación y especialmente

asimismo a que se comprometa a dotar a la comunidad autónoma de euskadi de un órgano dirigido a la coordinación y promoción de la actividad

hirugarrena a que se comprometa a seguir impulsando la adopción de todas las medidas necesarias al objeto de poder cumplir todos los requisitos exigidos por el instituto de salud carlos tercero para obtener la acreditación como instituto de investigación sanitaria durante este año

sobre el proyecto de construcción del nuevo edificio del instituto contando con los especialistas y agentes del entorno al objeto de poder adecuarlo a las necesidades reales que exige la investigación

en aras a contribuir a mejorar la salud de las personas en ese sentido se compromete a presentar en el plazo de cuatro meses en el parlamento vasco un informe que recoja las conclusiones y recomendaciones

señora presidenta señor lehendakari señor consejero legebiltzarkideok

los socialistas vascos venimos a esta sesión con ánimo constructivo y prepositivo

pero valga esta declaración de principios previa porque estamos ante un debate que el gobierno ha querido desvirtuar deliberadamente

un debate que el departamento de salud quiere recurrir a su

insiste una y otra vez en desdibujarlo quiere hacer ver que debe haber algunos intereses en la construcción de un edificio

cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de investigación el ladrillo sirve para dar cabida a la atención sanitaria

si no sirve para eso no queremos más ladrillos de hecho el grupo socialistas vascos

registró el pasado uno de marzo una iniciativa que como usted puede comprobar no hablaba de ladrillo hablaba de investigación biomédica

hablaba de un modelo de país que basa su desarrollo en el conocimiento y su aplicación al bienestar general exactamente lo contrario que el modelo del ladrillo porque esta ha sido una preocupación socialista desde el minuto uno esa y no el ladrillo el edificio

al punto que había merecido el respaldo expreso del instituto carlos tercero y de la unión europea no del grupo parlamentario socialista

quienes financiaron el proyecto y justificábamos aquella iniciativa en un recordatorio que hoy todavía tiene más validez euskadi ha realizado históricamente una fuerte apuesta

con una colaboración público privada este modelo se reforzó la legislatura pasada cuando el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico alcanzó según los últimos datos oficiales del dos mil once el dos coma seis por ciento del pib por encima de la media de la ue

por las administraciones públicas que han incrementado su apoyo a la iniciativa privada una de las áreas donde la extensión de ese apoyo era más notable ha sido precisamente la era sanitaria y así fue

el progreso del instituto biocruces el mayor centro de investigación biosanitaria de euskadi que tenía previsto abrir sus puertas en dos mil quince la fortaleza del proyecto estaba avalada como hemos señalado por el gobierno de españa a través del instituto carlos tercero que había concedido un crédito en condiciones ventajosas por valor de diez coma cinco millónes de euros y por las instituciones europeas

estos diecisiete millónes de euros públicos para construir el instituto biocruces

tenían una condición inicial que esté acabado en dos mil quince sin embargo el actual departamento de salud en su afán de paralizar las infraestructuras y fomentar las concertaciones con centros privados ha dejado en el aire este proyecto y con él

un proyecto de investigación médica con el agravante de que los diez coma cinco millónes de euros

al uno por ciento deberán devolverse con intereses de demora del ocho por ciento aproximadamente

estamos pendientes de una respuesta del gobierno precisamente para conocer este detalle

surgido por impulso de los propios profesionales sanitarios y no de clientelismo

supondría la pérdida de una oportunidad y un paso atrás en el compromiso de los diferentes gobiernos de euskadi para situar a la comunidad autónoma vasca a la cabeza de la innovación en este caso en un ámbito que afecta directamente a los ciudadanos

y por eso planteábamos que esta cámara respaldase expresamente el modelo de conocimiento basado en la investigación y el desarrollo en todos los ámbitos como motor de un modelo económico

como herramienta de creación de empleo de calidad y como instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos

los proyectos ya iniciados y que cuentan con garantías de financiación dirigidos a situar a euskadi como referente en la investigación y pedíamos una solicitud expresa para continuar el proyecto

y con elde el hospital universitario de álava y así

dotada de los recursos necesarios y que le permitiera convertirse en referencia internacional de investigación biomédica esta es la posición clara de los socialistas desde el principio lo conoce bien el departamento por mucho que el señor darpón

y la dimisión del consejo científico de biocruces es elocuente hoy mismo los sindicatos por lo menos también denuncia este mismo tema porque lo que denuncian no es que el departamento esté paralizando la construcción del edificio no

científicas las dotaciones materiales complementarias las colaboraciones estratégicas que convierten el instituto en referencia en investigación

es paralizar la investigación en euskadi por eso los socialistas hemos querido sumar con el apoyo de los grupos que han firmado la enmienda con nosotros

ese respaldo expreso a los proyectos científicos en marcha que se coordinaban hasta ahora en biocruces y señorías

a la enmienda que han aprobado ustedes señores del pnv que apoyan al gobierno y el inestimable apoyo de bildu

señor lehendakari con estos apoyos más vale tener oposiciones

dónde está ese compromiso en el presupuesto del dos mil trece es que hay algún compromiso no

el papel lo aguanta todo no entiendo cómo puede haber conseguido

el gobierno el punto tres dicen que van a hacer todo lo posible para cumplir

no hay acreditación si el proyecto científico no tiene una dirección científica la dirección científica tenía un proyecto y se ha ido tendrán ustedes que hacer un nuevo proyecto de investigación y sabe usted la acreditación

así que este otro punto vuelve a ser palabras vacías y cuarto punto

cómo se puede venir al gobierno sin tener reflexionado cuál es el programa de gobierno

y señor lehendakari quisiera decirle que usted probablemente se va a sentir muy satisfecho porque hoy va a conseguir una aprobación

han firmado ustedes y bildu yo en su lugar estaría muy preocupada porque una victoria parlamentaria no significa que vaya a ganar nadie porque mire usted en este caso se pierde biocruces se pierde un proyecto que va en favor de la salud de las personas y además con gran repercusión

van a perder los trabajadores en definitiva pierde euskadi

estaría hoy muchos más preocupado nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

ari garena desde el grupo parlamentario popular vemos con preocupación el futuro del instituto de investigación biocruces a raíz de los últimos acontecimientos y hechos que se van conociendo el último de ellos la dimisión de los tres científicos que conforman la dirección de este proyecto

a raíz de la información que ha recogido este grupo especialmente en los dos últimos días este instituto constituye una apuesta estratégica por la investigación e innovación y está llamado a ser uno de los más grandes de euskadi y un verdadero centro de referencia en el campo

el objetivo fundamental de biocruces es trasladar los avances de la investigación científica a la práctica médica asistencial con el objeto de conseguir una mejora en la salud de las personas el instituto biocruces es un centro de investigación que pretende desarrollarse según el modelo de institutos de investigación sanitaria propuesto por el instituto de salud carlos tercero

acreditación por este instituto el instituto carlos tercero como instituto de excelencia en la investigación biosanitaria

que se pueden perder si no está finalizada su ejecución para el año dos mil quince por un lado se ha obtenido una financiación por parte del gobierno central

de euros en tres fases seis millónes en dos mil diez

y dos millónes en dos mil doce también hay que decir que están pendientes de recibirse dos millónes de euros en dos mil trece este es un prestamo a quince años

veintidós por ciento a devolver a partir del año dos mil quince por otro lado está también la financiación a través de los fondos europeos

por un importe de seis coma cinco millónes de euros que también podría perderse si no llegan para este proyecto en concreto es decir estos fondos que llegan

españa si no se financia este proyecto en concreto el incumplimiento de las obligaciones de reembolso dará lugar a la revocación del prestamo y al reintegro del importe percibido más los correspondientes intereses de demora

conocimos la decisión de renunciar a la construcción del edificio que servirá de sede a este instituto

comunicada por el propio consejero en esta misma sede parlamentaria nos decía que en la actual coyuntura económica y para este departamento de salud

aconsejan retrasar este edificio quizá sí que es cierto que durante la ejecutiva anterior la legislatura anterior se podía haber acelerado más la ejecución

conviene recordar que la estructura física de un centro de estas características exige la existencia

exclusivamente a la investigación en primer lugar no entendemos dicho argumento cuando el gobierno vasco

y ya en segundo lugar si se trata de priorizar el gasto

debería haber sido una prioridad para este gobierno porque esto sí que es un proyecto de país posteriormente parece ser que el departamento de salud ha comunicado al equipo de dirección entre otras las siguientes cuestiones

el cese de la incorporación de investigadores de ikerbasque la paralización de la sala de terapias avanzadas con células madre además del equipo

del animalario como decía anteriormente el último hecho conocido es la dimisión presentada en bloque de la dirección científica ante la falta de un mínimo apoyo según ellos han manifestado por parte del departamento de sanidad es

pone en peligro la viabilidad futura de este proyecto señorías porque ya de lo que estamos hablando claramente es de que este proyecto se pueda paralizar y en consecuencia se pierda la financiación y la acreditación la acreditación de cada centro en un instituto de este tipo como he dicho anteriormente la realiza el instituto carlos tercero

publicada por dicho organismo con los pasos que están dando por este gobierno se pone en riesgo claramente la obtención de la acreditación y además de todo lo que puede significar en la proporción también de fondos que pueda recibir el instituto por tener esta acreditación señor

este gobierno tendrá que explicar por qué se han tomado estas decisiones

la viabilidad futura de un proyecto de estas características y que suponen un claro

un tren que no sabemos cuándo volverá a pasar

el lunes en la comisión de salud y consumo en la que esperemos

luego también tendremos la oportunidad de conocer las explicaciones de las personas que conformaban la dirección científica médica de este proyecto y que han dimitido como decía al principio de mi intervención va a salir una enmienda de transacción firmada por eh bildu y el partido nacionalista vasco

izango da como decía un acuerdo entre eh bildu y el partido nacionalista vasco en materia sanitaria llevamos dos plenos en los que el gobierno consigue salvar determinadas situaciones

no sé si en el futuro se van a poder reproducir estos acuerdos en materia

eh bildu estará ahí para apoyar al gobierno en muchas cuestiones que seguramente se susciten a lo largo de esta legislatura

en un proyecto estratégico de investigación y en dar a entender que quieren de alguna forma paralizar o

y en definitiva que pueden poner en peligro este proyecto

proyecto estratégico y de futuro y de país para nosotros eran esenciales y así lo reflejamos en nuestra enmienda

pero con todas las decisiones que hemos visto que se han ido tomando y con el último hecho conocido de la dimisión de la dirección científica creemos que se paraliza el proyecto que se ponía en peligro la acreditación creemos sinceramente que en estos momentos puede estar en peligro la acreditación del instituto carlos tercero y también otra de las cuestiones

previstos por ello hemos firmado este acuerdo con el grupo upyd y el partido socialista que creemos que contienen los aspectos fundamentales que defendíamos en nuestra enmienda presentada nada más muchas gracias

bukatuta egongo que el gobierno no pone dinero decía la señora garrido cómo se puede decir eso

concedido precisamente por el instituto carlos tercero pero sigue siendo un prestamo un crédito

un crédito de diez coma cinco millónes que en un principio respondía

del proyecto de la construcción del edificio de dónde se justifica que posteriormente el presupuesto ascienda a veintidós millónes

he de decir que nuestro grupo confía plenamente en la palabra dada por el consejero de salud

la continuidad del instituto biocruces entendemos

la investigación en biocruces no depende solo de la construcción o no construcción de un edificio

puede ser conveniente retrasar el inicio de las obras lo que no quiere decir que estemos en contra

de un nuevo edificio si así hiciera falta en ese sentido

modelo basado en la investigación traslacional así mismo instamos

sí muchas gracias presidenta yo comprendo que el portavoz del grupo nacionalistas vascos tenga que hacer el papelón que acaba de realizar y tener que defender al gobierno
vasco con las indicaciones que le habrá planteado lógicamente el consejero pero es ciertamente incomprensible que eh bildu

decida por razones desconocidas apoyar a este gobierno en un asunto tan sensible y tan fundamental para el futuro de euskadi como es este del que estamos

al gobierno haga todos los esfuerzos para defender la postura del gobierno lo que no se entiende es la actitud de eh bildu que

y a cambio de no sabemos qué decide finalmente a última hora

a un gobierno en su pretensión de laminar un proyecto absolutamente fundamental para euskadi por lo tanto deciden echar para atrás una

que no tenía otro objetivo ni tiene otro objetivo que defender el instituto biocruces edificio incluido porque este edificio es absolutamente fundamental

oponerse a plantear una exigencia contundente al nuevo gobierno en relación al proyecto biocruces y a la construcción del edificio efectivamente estamos hablando de ciencia y salud estamos hablando de innovación estamos hablando de investigación y desarrollo estamos hablando de investigación biomédica estamos hablando de un determinado modelo económico que nos permita salir de la crisis en lugar de copiar todo lo negativo que ha venido haciendo el gobierno de españa en los últimos tiempos este y el anterior era una gran oportunidad para que en lugar que

no dice nada sino que lo que demuestra es una confianza ciega en el actual gobierno hubieran puesto sobre la mesa a este gobierno para que se comprometa en aquello en lo que a día de hoy no se ha comprometido y por cierto sin este proyecto científico

por lo tanto la decisión del gobierno vasco paraliza la investigación en euskadi y los proyectos científicos necesarios con la opinión contraria de la comunidad

una decisión errónea más que una torpeza una grave equivocación es ciertamente curioso el mismo día

va a entregar cuatro millónes y medio de euros a un equipo de baloncesto este gobierno aduce

dificultades presupuestarias para incentivar la actividad económica para defender la salud para defender la innovación el mismo día o el día después que nos enteramos que la diputación foral de bizkaia con el dinero de los contribuyentes vizcaínos decide dar

el mismo día decide que no hay dinero para defender este proyecto absolutamente fundamental para el presente y el futuro de euskadi ciertamente lamentable estas

dicen mucho dicen mucho de lo que este gobierno o este partido político en este caso pretende hacer y en fin respecto a la enmienda transaccional que

pues lógicamente son palabras y son pájaros y flores y es una transaccional que

a un gobierno y en este caso para apoyar a un gobierno precisamente en aquello por lo que no ha mostrado ningún tipo de interés en estos meses de gobierno y así efectivamente se dicen cosas tan extrañas como instar

en fin contradicciones que demuestran que la única pretensión era firmar una transaccional para ayudar al gobierno y en se sabe exactamente qué o el tan manido y habitual

sobre el proyecto que también se plantea en esta transaccional

que este gobierno no apuesta por este proyecto lo que se le insta es a llevar a cabo una reflexión como si el partido nacionalista vasco no hubiera tenido tiempo de reflexionar en sus largos meses de oposición y en concreto

biocruces consigue y dispone del dinero que necesita

con la ayuda de eh bildu se lo impiden amparándose en la crisis el mismo día en que la diputación foral de bizkaia con el dinero de los contribuyentes vizcaínos concede

a un equipo de baloncesto nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

el equipo de dirección científica que ha diseñado el proyecto científico de biocruces hori da desberdintasun bakarra beste guztia berdin berdina da

señora ubera lamento tener que comunicarle que usted se ha confundido

coincide con lo que defiende el gobierno usted defiende el compromiso con la universidad

el mantenimiento del animalario el mantenimiento de la sala blanca

etcétera eso es precisamente lo que quiere romper el consejero

y por eso y como mayor ejemplo del fracaso ha sido la dimisión de la dirección científica así que señora ubera creo que se ha confundido tanto en lo que usted defiende que no coincide con el gobierno como en algunas cosas que yo creo que no están en el debate

estamos hablando de la defensa de un proyecto de investigación que se ha cargado directamente el señor consejero de sanidad

no vengan ustedes aquí señor orbegozo a enredarnos con que si hay un crédito blando que hay que pagar así o hay que pagar asau si eso no nos importa hay dinero para la financiación del proyecto y desde luego no es a precio de mercado

una financiación subvención a fondo perdido no vamos a enredarnos con eso

estamos hablando de un centro que contaba con una potente financiación con investigadores de primer nivel investigadores ikerbasque

quiere hacer desaparecer del proyecto biocruces contaba con un convenio con la universidad que el señor consejero prohibió taxativamente a la dirección científica continuar con él

con un proyecto científico que defendía el ahora dimitido comité

precisamente del señor consejero de sanidad aquí

y además con no muy buenas formas es que el señor consejero haya laminado

con unas formas impositivas con unas prohibiciones taxativas oiga usted se cree que se puede funcionar así señorías este no es un debate partidario

este es un debate de un proyecto muy importante de país que ustedes se han equivocado

desechado y por eso le digo señor lehendakari que no es para estar contento por el hecho de que usted hoy consiga

es para estar muy preocupado porque quien pierde es euskadi

la posición que sea pero por cómo han podido llegar a semejante posición

porque aquí no gana nadie y quien más pierde desde luego es la sociedad de euskadi y

desde luego lo que no nos ha faltado es información y me imagino que a usted tampoco

información sobre esta cuestión y a usted le habrán trasladado el tema de

el tema de los investigadores ikerbasque la unidad de medicina cuantitativa

han trasladado a lo demás por lo tanto usted firmando esta enmienda de transacción con el gobierno

las decisiones que ha tomado este gobierno el gobierno del partido nacionalista en relación a este proyecto y que van encaminadas a paralizar un proyecto de estas características y de

zerbait egin genezake baina azkenean ematen du aitzaki bezala ipini duzula decía el portavoz del partido nacionalista vasco que la palabra

nos van demostrando que este gobierno desde luego no tiene mucha voluntad de impulsar un proyecto de estas características desde el principio y la verdad

es favorable y tiene el viento a favor decía lo de un prestamo sí ya sabemos qué es un prestamo pero en unas condiciones muy favorables a ver cuándo este gobierno obtiene

de envergadura y proyectos estratégicos vamos a verlo vamos a verlo en un futuro y sabe que la revocación del prestamo va a llevar al reintegro del dinero percibido más los correspondientes intereses de demora por no hablar de los fondos feder

que son seis coma cinco millónes de euros porque iban para este proyecto en concreto es que esa cantidad se puede perder si no viene para este proyecto y sino pues infórmese señor

es así decía que la investigación no depende de la construcción de un edificio solo sí indudablemente puede depender de otras cuestiones pero usted

sobre cómo son estos proyectos de investigación concretos

que esto también depende el tener la acreditación correspondiente otorgada por el instituto carlos tercero dependía también de tener

unas salas concretas espacios bien definidos dedicados a la investigación los pasos que se han dado desde luego para nosotros

la acreditación y desde luego el proyecto en sí las dificultades presupuestarias no pueden ser la excusa

un proyecto estratégico de estas características porque yo le preguntaría directamente al lehendakari que está hoy aquí sentado acaso

si este proyecto estratégico que ustedes con sus actuaciones están paralizando

para este gobierno parece que a ustedes no les gusta este proyecto porque ustedes están cuestionándolo

desde el principio que han tomado posesión con todas actuaciones y con sus decisiones

tendrán que explicar qué razones ocultas están justificando la adopción de determinadas decisiones

a paralizar este proyecto el colmo sería

ha dicho que la enmienda de transaccionada quehemos acordado no decía nada exige compromisos concretos igual de respetables

la enmienda que han pactado ustedes cuando decía que sin proyecto científico no habrá acreditación estamos de acuerdo y precisamente

que no dependa todo la construcción o no de un edificio sino que la acreditación se base precisamente en su capacidad de investigadora decía que no hay dinero

enmiendas que eran pájaros y flores hablaba de grupos que apoyan ciegamente a un gobierno

con esas afirmaciones desde luego cualquiera que siga el debate parlamentario sabe que aquí no hay ningún grupo que apoye ciegamente al partido y menos eh bildu

la señora garrido cuando criticaba la falta de información puede ser que sea así pero bueno para eso están solicitadas las comparecencias tanto de consejero

de los agentes implicados en toda esta cuestión y antes la señora roncal hablaba de victoria parlamentaria de alianzas

sobre temas que son fundamentales para el desarrollo

garaia da por lo tanto nosotros lo que

es que mediante esta serie de acciones o mediante esta serie de compromisos que solicitamos que adquiera se logre que el instituto biocruces mejore su rendimiento

que se le habían asignado desde el primer momento siempre

de hecho entendemos que el centro últimamente ha sido una dirección

tanto en lo que se refiere a su estructura a las dimensiones

que plantea el proyecto etcétera

del consejero iban a ser una amenaza para el proyecto biocruces

de hecho creemos que la viabilidad del proyecto no pasa por la construcción o no de un edificio

la viabilidad del instituto biocruces entendemos que pasa por retomar la tarea de potenciar la competitividad de los investigadores clínicos en las convocatorias públicas y la investigación contratada no en si se construye o no un edificio

de la financiación lo que realmente es llamativo es lo que entienden algunos por crédito cuando vuelven a decir que el gobierno vasco no pone un duro y eso no es cierto

se da en condiciones ventajosas pero hay que devolver en cuando a los fondos feder entendemos que esos fondos no se pierden en ningún caso

a otro tipo de iniciativas por tanto

el apoyo decidido al igual que lo hace el consejero del instituto biocruces entendemos que la investigación en osakidetza y en biocruces no nace antesdeayer no nace hace dos años lleva años

en ese campo y que tampoco puede depender de la construcción o no de un edificio

se retrasa que en todo caso tampoco estaría terminado para el año dos mil quince por lo tanto

diferenciar el proyecto de edificio pero que es el proyecto de investigación

la decisión no es solo económica como algunos intentan una y otra vez

sino que entendemos que la estructura del propio instituto tal y como está planteado ahora mismo no se parece en nada

sanitaria de esta comunidad tenemos el ejemplo por eso por lo tanto

para evaluar el proyecto en su conjunto y una vez que finalice esa tarea

traiga las conclusiones para que se puedan debatir en el parlamento besterik gabe mila esker

sí gracias presidenta voy a intentar ser breve porque

un acuerdo tenemos una enmienda transaccional firmada que recoge lo que a día de hoy digamos que debemos instar al gobierno vasco a la espera de lo que pueda ocurrir en los próximos meses y

gobierno nos presente tal como ahí se pide el plan de competitividad y sostenibilidad que contenga medidas de choque para garantizar la viabilidad y el equilibrio operativo del bec y a partir de ahí seguir

deberíamos dar cuáles son las medidas que deberíamos impulsar para hacer viable esta

realizamos una interpelación al lehendakari hace tres semanas en relación a este asunto para que nos explicara las medidas que el gobierno vasco se plantea tomar

que los parlamentarios y parlamentarias conocen sobradamente es un asunto que viene de atrás y que en este parlamento

en diferentes ocasiones lo cierto es que

interpelación que el tribunal vasco de cuentas públicas certificaba la semana anterior a plantear esa interpelación la delicadísima situación económica en la que se encuentra

los problemas de la infraestructura pero no las cifras concretas de un agujero auditores solo ven una solución que aumente la aportación de dinero público pero lo cierto es que ni así quedaría garantizada su viabilidad a corto plazo lo cierto es que el informe fiscalizador del tribunal vasco de cuentas públicas sobre la actividad del recinto entre dos mil ocho y dos mil once

financiera y alerta de que sus gestores deben afrontar el pago de ciento cincuenta millónes de euros al vencer los plazos de dos créditos firmados la década pasada para afrontar la construcción de la feria lo cierto es que esta macroinfraestructura fue inaugurada en dos mil cuatro tras una inversión pública superior a los seiscientos millónes de euros una cantidad que la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco estarán pagando dos mil veintisiete invierten por lo tanto doce millónes anuales cada uno para afrontar el crédito contraído con el banco europeo de inversiones es decir doscientos cincuenta millónes de euros el problema es que quedaban pendientes otros dos créditos firmados con diferentes entidades financieras sin tocar y ahora podrían tener que hacerlo de golpe en dos mil cinco el consejo de administración pretendía sufragar los ciento cincuenta millónes extras con la venta de terrenos de la antigua feria de muestras de bilbao

compromisos que no se han materializado a la fecha del informe los gestores del bec también pensaban afrontar las citadas obligaciones financieras con los

lo cierto es que en sus nueve años de vida el recinto nunca números positivos en conclusión a día de hoy es urgente poner en marcha cuanto antes un plan de choque para frenar la sangría económica que rodea el bec para ver si conseguimos que sea

que tenga futuro y que sirva a los intereses de los ciudadanos vascos lo cierto es que la consejera en una reciente

pendiente y la previsión inicial de ciento cincuenta millónes de euros

que no se han producido pero también con los fondos obtenidos de la venta de los terrenos de la antigua feria internacional de muestras de bilbao cosa que tampoco se ha producido por tanto decía no se han producido ni unos ingresos ni otros y tenemos que abordar atendemos ese prestamo no podemos atender ese pago en el año dos mil catorce y lo que habría que hacer porque evidentemente no queda otra opción es renegociar este prestamo

millónes de euros decía que este consejo de administración último se celebró el día veintiuno de marzo y en el mismo se decidió que se reiniciara la renegociación de la deuda a través de una comisión que ya estaba operando previamente formada por una representante en este caso del gobierno vasco

un representante del consejo de administración y por el propio director

por lo tanto el asunto es qué hacemos a partir de ahora

tal como pedimos en esa enmienda de transacción un plan de competitividad que saque al bec de la situación en la que se encuentra y pueda

a los intereses de los ciudadanos vascos por eso pedimos en esa enmienda de

que ustedes tienen pedimos al gobierno vasco que durante el actual periodo de sesiones es decir antes del día treinta de junio elabore y presente ante esta cámara un plan de competitividad y sostenibilidad que contenga medidas de choque para garantizar la viabilidad y el equilibrio operativo

introducimos también lo que proponía el grupo popular que es instar al gobierno vasco a que ponga en valor la infraestructura no descartando alquileres o ventas parciales de la superficie inutilizada y en un tercer punto

a que respete escrupulosamente todas las regulaciones legales vigentes en sus procedimientos y especialmente los principios de publicidad igualdad mérito y capacidad en la contratación de personal porque también a este respecto había dicho algo el tribunal vasco de cuentas públicas diciendo

cumplido ni respetado escrupulosamente todas estas

legales en fin por lo tanto decía la consejera que el despliegue de este nuevo modelo que este gobierno quiere plantear a partir de ahora

y captar nuevos ingresos hasta alcanzar progresivamente un equilibrio prevemos decía que con este tipo de acciones podamos alcanzarlo en el ejercicio

debe contemplar una paulatina recuperación de la actividad y que en el horizonte dos mil quince dos mil dieciséis haga cuando menos que se produzca una recuperación económica y el bec pueda al menos si no generar excesivos recursos cuando lo menos cubrir los gastos que produce

es el objetivo que tiene esta moción firmada por la práctica totalidad de los grupos de esta pedir al gobierno que presente este plan existe un plan teórico desde noviembre del año anterior lo que se trata es que este plan recoja medidas concretas y actuaciones concretas para sacar

que encomendamos al gobierno que antes del treinta de junio nos traiga este plan para a partir de ahí podamos realizar el resto de grupos las aportaciones necesarias

compartimos que es salvar la situación financiera y económica en la que se encuentra dicho esto únicamente agradecer para terminar a los grupos que han firmado esta moción y las aportaciones interesantes que han realizado

muchas gracias señora presidenta yo tampoco me voy a extender mucho porque el otro día también en la interpelación que hicimos a la señora consejera

hablamos bastante sobre este tema y sobre un proyecto basado

en una falsedad inicial o en tres falsedades iniciales primero la necesidad de hacerlo segundo las previsiones de costos y tercero las previsiones de beneficios es evidente que no hacía falta hacer

es evidente que la previsión de costes ha costado más del doble de la previsión inicial que eran trescientos millónes de euros y de la previsión de beneficios que íbamos a tener pues no solo no hemos visto ninguno sino que cada año se incrementa y se duplica las pérdidas

de euros al año que por cierto serviría para hacer dos biocruces en un solo año

pero bueno esto es lo que nos estamos gastando al año en un edificio vacío

y como llevamos ya más de diez años hablando de planes de viabilidad de planes de competitividad de planes de choque que los sucesivos gobiernos iban a plantear y a traernos y esto iba a conseguir que

y obtener mayores rendimientos que los que se estaban obteniendo nosotros ya no creemos en eso gran cosa de hecho en el tiempo que ha transcurrido las ferias de profesionales en fin

en todo el mundo y además basta leer el informe del tribunal vasco de cuentas para darse cuenta

reunirse y ver los productos que tienen y lo que venden y por lo tanto lo que tenemos son

todo el parking que tenemos ahí debajo también medio vacío en el mejor de los casos

moción que se incorpora en la transacción es que este gobierno

es que sabiendo como sabemos todos

y dedicarlos a otras cosas y obtener beneficios y rendimientos bien sea

de muchos de miles de metros cuadrados vacíos todo el año o bien sea vender parte

que no se usa para nada pero que a los vascos nos cuesta mucho dinero y que como decía el señor maneiro el año que viene vamos a tener que devolver un crédito solo por esto de ciento cincuenta millónes de euros que el gobierno vasco no está ni en condiciones ni en disposición de poder

el año que viene y por eso no me voy a extender más nosotros lo que entendemos es que ya vale de y nos parece muy bien que se presente el plan de choque que planteaba la señora consejera el otro día a ver si mejora en algo los ratios

pero lo que exigimos ya a este gobierno es que

que paralicen la sangría anual de fondos públicos que se nos van en una

egun on guztioi yo sí me voy a extender un poco más porque creo que el tema lo merece y sí estoy satisfecho porque creo que

la crítica a la gestión realizada y la preocupación por el futuro

anterior ya a la interpelación de upyd pero por razón de tramitación parlamentaria se sustancia antes

que haya una anuncia en la cámara para mejorar

que es muy delicada yo me voy a extender porque además de ser delicada e intervienen dineros públicos es muy importante para bizkaia y para euskadi

una sociedad pública es el ejemplo del despilfarro y de la mala gestión del dinero público hau da

es una infraestructura con un coste desproporcionado y con una mala gestión que lo ha mantenido

con pérdidas de explotación sin plantear si quiera por sus responsables un plan

vamos a repasar un poco porque aquí se ha perdido muchos dinero público

solo funcionamiento de casi cuarenta millónes de euros estamos hablando de un promedio de cuatro millónes de euros de diferencia entre ingresos y gastos cada año

ese promedio ha sido de cinco coma cuatro millónes de euros o sea que el enfermo no mejora sino que empeora fíjense que no voy a darle vuelta si quiera a la deuda por ser importante ya se ha hablado por otros

y de que en dos mil catorce debe pagar un crédito de ciento cincuenta

hasta el dos mil veintisiete debe pagar unos ciento noventa millónes de euros más tendrá que refinanciar la deuda para solucionar todo esto

a mí me preocupa mucho ese promedio de cuatro millónes de euros de pérdidas anuales porque cómo va a cubrir

en dos mil trece por ejemplo si ya no tiene tesorería disponible si se ha comido incluso el excedente

la diputación foral y el gobierno vasco no con esa finalidad pero incluso está cubriendo con gastos corrientes

los gastos quiero decir corrientes con ese dinero que no deberían de ser utilizados para gasto público aquí se ha reprochado muchas veces la utilización para gasto corriente

lo está haciendo con absoluta tranquilidad pero se le acaba incluso eso se queda sin tesorería qué va a hacer y qué presupuesto

lo va a cubrir son unas pérdidas enormes y crónicas sin que en estos diez años de vida del bec sus gestores

y esta es la cuestión de fondo la gestión es lo que debe de preocuparnos porque si no hay un cambio de rumbo

el déficit es incomprensible señorías que durante años a pesar de las pérdidas no se haya hecho un plan para hacer viable esta infraestructura

la pasada legislatura el gobierno vasco solicitó en reiteradas ocasiones que se elaborara un plan de viabilidad

llegara a hacerlo hasta finales del dos mil doce por lo menos

don josé luis bilbao para emplazarle a presentar un plan estratégico que no se limitara a explicar cómo renegociar la deuda de la sociedad con las entidades financieras sino en ajustar y cito textualmente los excesivos gastos corrientes planteando reducir progresiva

pues como hacen todas las empresas porque una época en la que las empresas están sufriendo

ha permanecido impávido es cierto que ha disminuido la actividad ferial

les ha disminuido la actividad y sus pedidos solo que cuando cae la actividad

e intentan reorientar su actividad buscando nuevos mercados

lo de pelear para conseguir que los gastos igualen a los ingresos no ha ido con sus gestores ni con quienes tenían el poderde decisión así a pesar del déficit crónico mantienen unos gastos de personal que rondan los cinco millónes de euros lo que incluye el salario del consejero delegado

que en dos mil nueve era de ciento doce mil euros superior al del lehendakari y en dos mil diez cuando se le exigió una bajada como al resto de las administraciones públicas se bajó

euros y tengan ustedes en cuenta que la retribución máxima de los directivos

es la retribución que corresponde a un viceconsejero no más otra irregularidad muy graciosa en el sentido

cumplen esos excesos por todo eso el gobierno anterior le volvió a pedir un plan de negocio al señor bilbao que debía presentar en el mes de marzo de dos mil doce hace un año y aún andamos pidiendo hoy aquí un plan eficaz y concreto para salvar al bec porque se elaboró un plan que no concreta casi nada

el déficit de explotación a cero y precisamente por eso estamos hoy aquí pidiendo

porque si estuviera hecho algunos dicen que no sería necesario esperar hasta el verano para tenerlo y eso porque el grupo socialista ha introducido en esta enmienda de transacción el treinta y uno de junio como fecha límite bien háganlo pero háganlo ya porque el enfermo

a la espera supongo de concretar las actuaciones para salir de la situación en la que se encuentra

han estado desde su creación en manos de responsables institucionales del partido nacionalista vasco porque el pnv ha tenido siempre el noventa y siete por ciento de la capacidad de decisión

tenía mayoría para seguir haciendo como hizo lo que

no hacer nada y vivir cubrir su déficit de los fondos públicos porque

lo que no es responsable es no haber atajado el déficit crónico

siquiera y es mala gestión no solo en aspectos dinerarios

dice que la construcción estaba presupuestada en trescientos cincuenta millónes y costó quinientos cincuenta y dice también el tribunal que no le consta la aprobación de un plan financiero que contemple las previsiones de pagos a realizar y hace advertencias incluso en el último informe que

irregularidades en los procedimientos de concentración por eso estamos aquí hoy también no sigo

el bec es una infraestructura que existe y hay que lograr que sea rentable es importante para bizkaia y para euskadi

una carga por eso los socialistas apoyaremos aquellas iniciativas que permitan su supervivencia porque creemos

para la economía vasca pero habrán de ser propuestas que aborden el problema de la mala gestión de forma decidida

los socialistas exigimos una reducción drástica aunque progresiva de gastos de todo tipo de forma que se elimine al menos el déficit de explotación para ello

lo que sea necesario pero afronten con profesionalidad y decisión

porque no podemos seguir tirando el dinero y por ahora a la espera de otros comentarios

el bilbao exhibition centre es una infraestructura totalmente necesaria y fundamental para este país para

y para toda la sociedad en general en eso creo que sí que estamos de acuerdo todos los grupos así como también en la preocupación y ocupación

a parte de en una infraestructura fundamental también en una infraestructura sostenible en su actividad originaria y sostenible también en el tiempo

y por nuestros representantes institucionales tanto en juntas generales de bizkaia como en esta

su situación económica también en el día de hoy hemos podido escuchar

las causas de las dificultades para llegar a ese umbral de sostenibilidad parecen claras y compartidas por todos y por todas la explotación comercial del bec en el modelo actual aun siendo muy importante no consigue llegar a la prevista por lo que no se genera

suficiente como así bien dijo la consejera y tampoco puede sufragarse una parte de la deuda con la venta de los terrenos de la antigua feria de muestras porque fueron destinados a otros usos sociales como es la universidad del país vasco y san mames barria en mil novecientos noventa y siete se consideraban las ferias comerciales como el mejor lugar

han pasado ya dieciséis años y el mundo ha cambiado las tecnologías lo han hecho cambiar desde el año dos mil seis el estado español es el tercer país

en el mundo solo por detrás de china y estado unidos y desde el año dos mil ocho

que más ha decrecido en metros cuadrados utilizados comercializados en exposiciones un veintiocho por ciento notablemente

de los países de la zona euro italia y alemania un cinco por ciento francia un ocho por ciento mientras que china y brasil crece en metros cuadrados utilizados en un seis por ciento y un cuatro por ciento respectivamente

la coyuntura es muy complicada lo sabemos todos

europea por supuesto que sí que se van a necesitar todas las manos a la hora de remar totalmente sí indudablemente

necesarios porque son una realidad la mala situación económica general que estamos atravesando está afectando también negativamente al bec este no es un problema exclusivo del bec es un problema que afecta al conjunto del sector

nahi ditut decía que vuelvo a las coincidencias que en análisis previos en esta cámara hemos compartido el modelo ferial está evolucionando

nuevas tecnologías relacionadas con la maquina herramienta o distintos promocionados en el caso del turismo por poner dos ejemplos hoy siguen siendo necesarias pero en menor medida gracias a los avances en materias de comunicaciones hoy se expone en estas ferias sí pero también se presentan los productos mediante las nuevas tecnologías

y con posibilidad de encontrar la tecnología necesaria para el producto o para la promoción de un destino turístico más allá de los espacios

también se abren nuevas oportunidades hoy el mercado es global y cuando en aquellos mismos años mil novecientos setenta mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa

de negocio de perfil geográfico muy específico hoy tenemos las puertas abiertas para conocer cualquier producto comercial del mundo y también para que nos conozcan

con las necesidades cumple con estas dos visiones desde el pensamiento sobre lo que debería ser una feria expositiva al uso

del sector en un futuro eso sí debemos ajustar inmediatamente el rumbo financiero de esta infraestructura en un entorno además de especial

de ingresos del veinte y veinticinco por ciento en la facturación de las ferias del entorno en los últimos ejercicios yo creo que estamos todos de acuerdo y tanto la diputación foral como el gobierno vasco como la propia dirección del bec están en ello sailburuak oso ondo esan zuen pasa den astean

sí gracias presidenta de manera muy breve básicamente para agradecer a los grupos las enmiendas que han planteado a los grupos que han firmado esta

y al conjunto de los grupos que van a votar finalmente esta enmienda de transacción que esperamos

yo creo que todos estamos básicamente de acuerdo en algunas cuestiones se diga o no se diga yo creo que estamos todos de acuerdo en que la situación financiera

creo que estamos básicamente de acuerdo en que estamos hablando de una infraestructura faraónica gigantesca con un tamaño desproporcionado

y que efectivamente nos está costando un ojo de la cara creo que se diga o no se diga estamos todos básicamente de acuerdo

desde su construcción creo que se está poniendo de manifiesto que muchas cosas se hicieron mal y que efectivamente como decía nos está costando un ojo de la cara y creo que estamos todos básicamente de acuerdo se diga más o menos o no se diga

ha sido nefasta la gestión llevada a cabo durante todos estos años aunque quizás esa gestión

dada la infraestructura y las características de las que estamos hablando la señora corrales decía que esta infraestructura es fundamental para euskadi

una frase del señor reyes cuando decía

estoy bastante de acuerdo con esa frase más que con la de señora corrales el bec a día de hoy es una infraestructura que existe

dar todos los pasos necesarios aunque sea muy complicado para sacarla de esta situación se decía aquí que no es tiempo para la crítica pero desde luego siempre es tiempo de mirar atrás observar qué es lo que se ha hecho e intentar no cometer los mismo errores que en el pasado más o menos reciente

errores impulsados por políticos manirrotos que en lugar de creer o saber que estaban manejando dinero de los ciudadanos

dinero que no era de nadie creo que esa es una asignatura que a día de hoy sigue pendiente en euskadi no digamos ya en el resto españa pero aquí también se ha gastado mucho y mal

lo que ahora se plantea es instar a este gobierno a que presente

y sostenibilidad que la señora corrales definía además como definitivo y detallado en fin que recoja medidas concretas y positivas para darle la vuelta a esta situación sin excluir porque además así está recogido

del grupo popular sin descartar digo alquileres o ventas parciales de esta infraestructura en todo caso una vez que este plan se presente

infraestructura necesaria y fundamental nos decía la señora corrales

internacional de muestras de bilbao eso sí era fundamental aportaba y era rentable alguien decidió

que era porque hacía falta más espacio que luego se nos reconfirmó que eso de hacía falta más espacio tampoco era cierto

de gestión y de decisión política desde el minuto uno que fue la primera hacer esa pedazo infraestructura no necesaria inicialmente en ese momento

nos decía la señora corrales y tiene razón que en el año mil novecientos noventa y siete cuando se plantea hacer todo esto

ahora alguien tendría que explicar alguna vez

en juntas de bizkaia y en este parlamento cómo es posible el metro cuadrado de la de bilbao costara el doble que la de madrid la ampliación cómo es posible que un presupuesto de

nueva esa infraestructura en trescientos millónes si contamos el valor de los terrenos se va a más de setecientos

es que costó el doble que la de madrid por lo tanto supongo que en madrid tienen la mitad de intereses y de deuda que tenemos nosotros y eso a efectos de gestión y de costo se nota mucho

por fin en que hay que hacer algo porque llevamos diez años pidiendo planes incluso llegamos a plantear que se invierta

estoy hablando de hace cinco o seis años nosotros pedimos desde esta tribuna

que se dotara ese plan de bec para poder llevarse a cabo porque aquí se hacían planes y luego

la semana pasada y lo que llevamos oyendo de

son las mismas que todos sabemos que llevamos oyendo y diciendo todos los responsables en el tema de lo que había que hacer y que evidentemente no se ha hecho pero yo creo que todos somos conscientes hoy en día que tenemos una

en la que nos sobra más de la mitad de esa superinfraestructura

al tema ferial y por lo tanto lo que toca hoy en el año dos mil trece es que este gobierno se ponga las pilas y empiece a adoptar soluciones que enmienden los errores de los gobiernos anteriores y de quienes han dirigido

de una forma tan nefasta porque hay que decirlo así porque peor no se podía haber dirigido

un sobre costo de obras no se podía haber dirigido peor porque estamos perdiendo es que en el año dos mil doce se pierde casi el doble que en el dos mil ocho o sea

la caída según el propio tribunal vasco de cuentas es brutal es

se ha hablado con mucha gente supuestamente se ha viajado por el mundo y se han llegado a acuerdos

y que por lo tanto a esa infraestructura tendremos que darle una solución satisfactoria para el bolsillo de los vascos que somos al final todos los que lo pagamos

esta infraestructura pues serviría para hacer muchas cosas y nos podíamos haber ahorrado el debate

porque podíamos hacer dos biocruces al año por toda euskadi nada más y muchas gracias

señora corrales tiene razón ha disminuido la actividad ferial

apuntan hacia ello pero eso no tiene nada que ver

con un tamaño enorme como eventos deportivos como espectáculos

y nada tiene que ver con la justificación de que los terrenos previstos

en la parcela de san mamés para contribuir no para contribuir a amortizar capital

es decir esos terrenos que no cubren todas las necesidades de amortización de créditos en absoluto porque había otros factores que usted sabe también que había que añadir entre ellos unos beneficios de la sociedad que no se han producido se producen perdidas no solo no se pueda amortizar de la manera prevista sino que hay que cubrir el déficit

se dijo también aquí por la consejera en la interpelación del viernes pasado no sigan diciendo que esos terrenos son responsables

y las instituciones si ponen esos terrenos en un sitio aportaran capital por otro

dinero sistemáticamente eso es lo importante y eso es lo que está ocurriendo por ejemplo fíjese en dos mil nueve

siete coma ocho millónes nos encontramos que tenía de perdidas

lo que hizo levantaba señales de alarma y que el consejero de industria el señor unda reclamará constantemente se abordará pero es que en el dos mil once seguían igual cinco coma ocho millónes de perdidas cinco coma ocho sin hacer nada sin hacer nada por eso digo que

he explicado en este caso señor damborenea de que es una infraestructura sobredimensionada y no se puede decir

no podemos remitirnos solo a ferias los mismos responsables que tienen decisión sobre el bec son los que han decidido la ampliación del euskalduna el año pasado

o del palacio de deportes de miribilla los mismos responsables el mismo partido político

para espectáculos deportivos competencia con el bec pero vamos a ver es que no puede el partido nacionalista vasco planificar las infraestructuras

por lo menos para hacerlo viable es que siguen generando infraestructuras que compiten entre sí en la misma zona geográfica aparte que son enormes que afectan al país pero eso sin hablar de landako en

entonces por favor yo por eso pedía también mi proposición no de ley y

que se haga así también en la transacción la comparecencia aquí para dar explicación de lo que se va a hacer mirando al futuro claro aparte hay que dar explicaciones políticas es que es mucho dinero público

hasta ahora ha sido el señor bilbao de la última etapa larga es el responsable de lo que ha ocurrido y ahora la consejera

del gobierno vasco de desarrollo económico ha tomado esa responsabilidad

y estaremos pendientes de cómo se lleva a cabo y de cuál es el plan para hacerlo y para acabar le diré que de todas maneras la actividad ferial ha bajado

ficoba una feria en irun la feria internacional costa vasca

ha tenido beneficios se financió prácticamente sola pero de forma dimensionada mire cuando se creó únicamente obtuvo

y dos millónes de la diputación foral de gipuzkoa que se salió lo dejó y ya no supo nada más y está amortizando el ayuntamiento a su costa

euros año y con beneficios y resulta sabe que el noventa por ciento aproximadamente de las ferias

eso sí es un problema de dimensión uno es rentable el otro es una ruina para los fondos públicos y no entiendo entonces ya lo preguntaré aquí a la consejera por qué razón en los presupuestos previstos para este año del gobierno vasco ficoba no recibe nada pero claro sigue recibiendo veinticuatro millónes de euros doce de la diputación y doce del gobierno vasco que está bien

no matemos al que hace bien las cosas gracias eskerrik asko reyes jauna

mire señor reyes no se lo he dicho en la primera intervención porque

se ha olvidado usted de los últimos cuatro años quién ha gobernado este país

quiénes eran consejeros y consejeras del consejo de administración del bec el gobierno vasco anterior no ha tenido responsabilidad alguna

por lo tanto no venga usted aquí achacando errores de gestión y fracasos de gestión

gobiernos anteriores al que ustedes tuvieron los últimos cuatro años no se atreva a hacerlo porque sabe usted que es totalmente incierto josé luis bilbao presidente vicepresidente el señor unda consejeros pilar zorrilla ignacio alday y tontxu campos

miembros del partido socialista ustedes tuvieron responsabilidad absoluta también al igual que el partido nacionalista vasco los últimos cuatro años gobernados por ustedes ustedes tuvieron responsabilidad por lo tanto no sean cínicos y no vengan aquí achacando responsabilidades a otros grupos o a otros partidos políticos

el bec no creo que reyes jauna ez zaude hitzaren

asumir que venimos de una época de bonanza en el que el recinto ferial se comportaba con unas pautas determinadas

se desplomaron hay que reconocer y así lo ha dicho la señora consejera que el bec es un recinto único en el arco atlántico también reconocemos que es una mole que tiene ciento cincuenta mil metros cuadrados y que es muy complicado

el año hay que modernizarlo hay que abrirlo al mundo hay que captar otro tipo de exposiciones otro tipo de actividades se le va a dar un nuevo impulso la situación actual hay que reconocer también que es pesada para las instituciones pero sin el bec la situación de euskadi la situación comercial

sería otra muy diferente a la que es actualmente se han hecho ustedes

al respecto la caída de la actividad exige nuevas medidas de choque para garantizar la viabilidad y el equilibrio de las cuentas

defendemos esta infraestructura como esencial para el conjunto del tejido económico vasco y por ello tanto el gobierno vasco la diputación foral y el propio

en adoptar medidas correctoras y nuevos planes para optimizar y rentabilizar esta infraestructura existe un máximo compromiso un compromiso estratégico e institucional para con esta infraestructura el bec es una realidad activa

del estado tal y como publica la página web de la asociación española de ferias

el veinticinco por ciento de las mismas tres ferias de doce en este mes de abril todas relacionadas con la industria pesquera y a esas

ferias relacionadas con la industria pesquera también añadirle un concierto

no pero se trabaja en una coyuntura adversa como ya he dicho en mi primera intervención y en esta segunda intervención no entendemos posible la realidad

y de la coyuntura de este es decir entendemos el bec como el soporte donde posibilitar

entre otros usos sociales y culturales por supuesto

de productos de nuestras empresas pero también creemos que es el último eslabón de la cadena desde mi posición de parlamentaria

creo en una nueva reindustrialización de euskadi necesitamos invertir en investigación necesitamos invertir en desarrollo necesitamos centros

globalmente sostenible necesitamos conocer nuevos productos que mejoran

y que conozcan los nuestros también fuera pero también atrayéndolos mediante certámenes a nuestro entorno natural en este mundo globalizado necesitamos darnos a conocer euskadi necesita

que en absoluto ha servido para crear empleo y reactivar la economía y por el contrario

ha derivado en la supresión de derechos laborales un aumento de la precariedad laboral un aumento en la tasa de desempleo aumento de los despidos además de los despidos baratos aumento de los expedientes de regulación de empleo y un empeoramiento muy significativo de las condiciones de trabajo una reforma que acaba con el marco de la negociación colectiva

una de las modificaciones incluidas en esta reforma es la relativa a la resolución de conflictos en caso de discrepancias

de trabajo establece que en el caso de desacuerdo entre la empresa y los trabajadores estas discrepancias se resolverán en la comisión consultiva nacional de conflictos laborales mediante el arbitraje obligatorio

antes de finalizar la legislatura estando el gobierno socialista en funciones elaboró un proyecto de decreto de creación de una comisión

sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos o la homóloga a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos en madrid

se pretende aplicar en euskadi uno de los elementos de la reforma de rajoy que más atenta contra el derecho a la negociación colectiva el arbitraje obligatorio en caso de conflicto entre las partes

obligatorio permitirá a la patronal inaplicar los convenios colectivos ya que somete a las partes

decidirá o mejor dicho impondrá las condiciones establecidas en la reforma laboral nosotras décimos que en el ámbito de la capv ya existía un procedimiento voluntario

entre las partes todavía hoy no entendemos muy bien por qué el gobierno socialista justo antes de

decide elaborar este proyecto decreto cuando antes ya había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad sobre la propia reforma laboral reforma que establece esta fórmula de arbitraje obligatorio en la resolución de conflictos

esta comisión de arbitraje obliga a un árbitro ajeno a las partes

a que decida en menoscabo siempre de la negociación entre las partes interesadas

claro contra uno de los derechos fundamentales como es el derecho a la negociación colectiva

en esta proposición no de ley lo que solicitamos a este gobierno

aurre egiteko dejará de existir la negociación

se le ha puesto en bandeja el instrumento tantas veces solicitado para cometer este nuevo ataque

cómo se va a blindar jurídicamente el marco vasco de negociación colectiva vasca denok ulertzen dugu egoera larria dela

bueno muchas gracias presidenta buenos días lehendakari buenos días señorías

con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por el grupo eh bildu sobre el abandono del proyecto de decreto elaborado por el gobierno para la constitución

por el incumplimiento de los convenios colectivos redactado por el anterior gobierno vasco que se encuentra en estos momentos en fase de elaboración de informes y contactos entre el gobierno y los agentes sociales así como defender en su lugar la enmienda transaccional

consideramos que es importante que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados artículos de la ley tres barra dos mil doce aborda un proceso de conversaciones y negociaciones con los representantes sociales al objeto de constituir en euskadi un órgano alternativo de la resolución de desacuerdos en la negociación colectiva que evite tener que recurrir a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos pero insta a la reforma del estatuto de los trabajadores el parlamento vasco inste al gobierno vasco y demás agentes sociales a consensuar unos mínimos comunes para la resolución de los desacuerdos en la negociación colectiva y en el supuesto

entre los representantes de las partes y voy a explicar por qué la ley tres barra dos mil doce de seis de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral contiene

elementos de ruptura muy importantes sobre los procesos reformadores precedentes y trata de ampliar los espacios de decisión del empresario en la contratación la gestión del personal y el reajuste de efectivos en su preámbulo la ley reconoce que esta reforma

pero no solo proclama pretender crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar

sino que da un paso más haya que marca una gran diferencia

y los inversores esta referencia a los mercados e inversores marca la ruptura entre las anteriores reformas laborales y la reforma del dos mil doce desplazando el objeto tradicional del derecho del trabajo la tutela del trabajo

de la empresa y de la productividad lo que implica un cambio significativo del enfoque en la aplicación de los espacios de decisión unilateral del empleador tanto en la flexibilidad interna

y traslada a los trabajadores riesgos de la situación y desarrollo de la empresa

en dos mil doce ha sido ampliar los mecanismos a través de los cuales los empresarios pueden adaptar incluso disponer de las condiciones de trabajo de sus trabajadores por medio o a pesar de la negociación colectiva a nivel de la empresa ello ha tratado a través de tres medidas fundamentales uno

en la empresa del convenio colectivo en vigor dos establecer ex lege la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en determinadas materias tres suprimiendo la ultractividad indefinida de los convenios colectivos

aunque se trata solo de tres medidas concretas las mismas trastornan profundamente el sistema precedente de relaciones laborales y de negociación colectiva amplían

a nivel sectorial e interprofesional sigue en pie la regla de que los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación

su tiempo de vigencia pero los negociadores pueden salir de ese círculo impuesto cuando la aplicación del convenio superior pueda ser más perjudicial que ventajoso esto es lo que se conoce como el descuelgue salarial por causas objetivas que puede referirse a materias concretas cuando concurran razones económicas técnicas organizativas o de producción y no solo económicas como hasta ahora

de los trabajadores antes de que venza el convenio colectivo y se elimina la traba que suponía la facultad de los convenios superiores de establecer condiciones para el descuelgue y ahora se garantiza ese derecho en todo caso

reconocido en el convenio de superior rango el descuelgue solamente

a una serie de materias pero son las más relevantes de toda la negociación

funciones y mejoras voluntarias de la seguridad social el procedimiento de descuelgue es el siguiente

si se alcanza un acuerdo se presume que concurren las causas que autorizan el descuelgue

las partes pueden someter sus discrepancias a la comisión paritaria de convenio y si no alcanza acuerdo en su seno

los procedimientos previstos en el convenio y puede también someterse

o los órganos previos en las comunidades autónomas en función del territorio afectado por el conflicto cabe así mismo el sometimiento de la cuestión a decisión de un arbitraje se ha facilitado así

la inaplicación en la empresa de reglas establecidas en los convenios colectivos vigentes si bien es una inaplicación temporal que rige hasta la extinción de este convenio colectivo por otro lado

la falta de acuerdo ya no bloquea o impide el descuelgue pero ha dado un paso mucho más haya en la reforma laboral del gobierno de rajoy desconfiando de los mecanismos autónomos y solución de conflictos colectivos en caso de no resolverse el desacuerdo en vías autónomas prevé a petición de una de las partes

obligatorio y vinculante ya sea en la comisión consultiva nacional de convenios colectivos que hasta ahora era un órgano tripartito de carácter consultivo

los cuales a su vez podrían delegar en un árbitro si no resulta por supuesto este punto inconstitucional y por qué digo esto

ha dicho la representante de eh bildu el partido socialista como los sindicatos

por entenderlo contraria a la autonomía de las partes

se encuentran recurridas ante el tribunal constitucional y en el orden contencioso administrativo respectivamente no obstante las reformas en este caso

aunque en la reforma del dos mil doce no se establecía un plazo determinado

de las comunidades autónomas el gobierno de españa al ver que no se estaban creando esos órganos tripartitos qué es lo que ha hecho ha dado

aprovechando que se acaba una norma que no tenía nada que ver con el tema pero ha aprovechado y ha metido una disposición adicional sexta

sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad

no hubiéramos constituido y puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente

colectivos o suscrito un convenio de colaboración con el ministerio de empleo y seguridad social acordando la actuación de esta comisión en el ámbito de las comunidades firmante directamente la comisión consultiva nacional de convenios colectivos puede subsidiariamente

conocer las solicitudes presentadas por las empresas y representantes legales de los trabajadores y por tanto asumir el arbitraje obligatorio directamente a partir de esa fecha

podríamos haber seguido aplicando lo que veníamos haciendo hasta ahora y pudiendo acudir a arbitrajes voluntarios pero este procedimiento ha cambiado con este cambio último

las partes pueden acudir directamente a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos para pedir el arbitraje obligatorio señorías esto es lo que hay

esta postura no sirve para nada en estos momentos porque estamos en otras reglas del juego por tanto termino defendiendo lo recogido en la enmienda transaccional firmada por el grupo socialistas vascos y el grupo nacionalistas vascos

que dicho órgano pudiera implicarse en poder establecer limitaciones en causas y procedimientos que pudiéramos establecer aquí algo diferente

el desequilibrio establecido con la reforma en esta materia haciendo un órgano distinto que pudiera mejorar las consecuencias de la reforma en este ámbito

del problema añadido que tenemos ahora dado que las organizaciones empresariales en estos momentos no están muy dispuestas a renunciar a las ventajas